con un cuarenta por ciento de profesorado en régimen de provisionalidad

de nuestros niños y niñas seguir su educación si cada vez que van a un centro educativo se encuentran con referentes diferentes cómo podrá el profesorado

si carece de la estabilidad necesaria para hacerlo cómo finalmente podrá el sistema educativo vasco en su conjunto cargar con la pesada mochila

hemos comenzado el curso escolar señorías con un treinta y cuatro por ciento de interinidad que sumado a los funcionarios provisionales

y estas son cifras intolerables la educación vasca es una educación de calidad de progreso pero ciertamente la educación pública tiene viene manteniendo

y si en un momento la pasada legislatura logramos reducir de un veintisiete por ciento de interinidad

a pesar del acuerdo regulador del acuerdo que mi predecesor y el sindicato comisiones obreras hicieron para tener opes consecutivas

hoy está como ven ustedes en un treinta y cuatro por ciento por qué

el dos mil trece y el dos mil catorce sin oferta pública de empleo ni tampoco se han tomado otras medidas de estabilización del personal por tanto

lo hemos traído los socialistas como preocupación y ciertamente hemos conseguido como probablemente también las personas que van aquí a debatir saben hemos conseguido una transacción con el grupo eh bildu nos va a permitir solicitar al gobierno una amplia oferta pública de empleo y además que negocie y acuerde

representantes de los trabajadores cómo sacar sino una oferta pública de empleo de otra manera oiga los representantes de los trabajadores tienen que ser escuchados y tiene que negociar con ellos tiene que haber encuentros con ellos y también con otras cualesquiera instancias

con el procedimiento por lo tanto si tiene que el gobierno

porque montoro es el que también está abriendo determinadas posibilidades más allá de las tasas de reposición que todos conocemos miren ustedes señorías este asunto es tan importante como que

informes expedientes resultados de investigación afirman que la estabilidad del profesorado no solo es una cuestión que afecta a la satisfacción del trabajador que ya sería muy importante

a la calidad del conjunto de la educación recientemente el mismo trabajo que pusimos en marcha en dos mil doce y cuyos resultados ha recibido

me estoy refiriendo al estudio caracterización y buenas prácticas de los centros escolares de alto valor añadido un estudio trabajado por la universidad del país vasco

afirma con toda rotundidad que sobresale como buena práctica el núcleo de profesorado estable que coopera con el funcionamiento del proyecto del centro que define

y una actitud positiva de pertenencia al centro y que sirve de base para la continuidad y la cohesión ante la llegada del profesorado nuevo

que oferta sin ningún tipo de esfuerzo la red concertada sin ningún tipo de esfuerzo porque obviamente trabaja sobre los mismos profesionales que generalmente ha contratado y

y que sin embargo cuesta extraordinario esfuerzo mantener en la oferta de la educación pública esta es una diferencia que actúa como hándicap a la hora de ofertar

en pie de igualdad lo que es la educación pública porque es muy importante mantener esos referentes estables entre los profesionales que conocen

lo que significa un trabajo de coeducación de educación en el que se implique a los padres y a las madres baina aurreko legealdian irakasleen

dakarkion ezinbesteko kaltearekin realizamos señorías un importante esfuerzo tomamos el tema de la estabilidad del profesorado como uno de los puntales uno de los objetivos importantes

del impulso de modernización de nuestra educación estaba el de tratar de mantener la estabilidad de los equipos docentes de las plantillas

que lleva dos años ya necesitado de actualización

no ha recibido una mirada por tanto si bien en la legislatura pasada logramos adecuar las relaciones de puestos de trabajo

logramos reducir como les digo también ese índice de interinidad y convocar ofertas públicas tres una cada año

lo que pedimos al gobierno no es que haga algo que nosotros no pudimos hacer

por lo menos lo que pudimos hacer no más si hace más mejor pero lo que pudimos hacer sí que nos sentimos legitimados

también de este gobierno por tanto como les digo señorías este es un problema importante no podemos iniciar cursos escolares con

que no tienen un puesto definitivo de trabajo

mucho profesor siendo inestable en el sistema unos serán obviamente de sustituciones

hay que modificarlo es muy importante tomarse la estabilidad del profesorado como puntal

firmado una transacción con como digo eh bildu que tiene vocación de recibir el respaldo de la mayoría de esta cámara por que lo que pide es

pública de educación amplia porque si hiciéramos una oferta publica que sumara

señorías es que ni siquiera llegaríamos a compensar los quinientos que se jubilan cada año con lo que el índice de interinidad

esta es una cuestión muy importante a la hora de negociar y a la hora de negociar con montoro con el gobierno de españa una cuestión que parece preocupar al gobierno

tiene que formar parte del núcleo esencial

qué curioso con mayor índice de interinidad del estado y esta es una cuestión importante y además con una capacidad de autoorganización

los que me repliquen también lo tengan en cuenta que tengan en cuenta todos los datos mire usted

ningún dato oculto para la replica que tengan en cuenta todos los datos

empieza a trabajar de distinta manera con aquellos que han tenido un cumplimiento del déficit y nosotros hemos cumplido los requerimientos del déficit

tenemos estado de extrema necesidad hemos cumplido los requerimientos del déficit estamos a la cabeza de la interinidad de todas las comunidades tenemos además cómo no apelar a ello una capacidad de autoorganización

y a mí me parece que todo eso son requisitos importantes a la hora de negociar pero claro a la hora de negociar también hay que negociar lógicamente con las centrales sindicales con los representantes de los trabajadores

un plan oiga un plan integral un plan que nos permita no solamente ofertar este año sino este año y sucesivos porque sino otra vez se nos volverá a acumular el trabajo se nos amontonará otra vez la interinidad tendremos que trabajar

como se ha venido por eso digo que no pido nada que nos haya hecho ya

no solo nosotros desde el gobierno lópez sino nuestros predecesores también por tanto

lo mejor de nuestras costumbres lo mejor de nuestro patrimonio para seguir avanzando

no pensemos que porque ya se ha puesto tasa de reposición del diez

ya se ha acabado la negociación si todavía no la hemos empezado señorías y no se olviden ustedes de que en su recuento además

en ese recuento preliminar que parecen hacer están especulándolo sin tener en cuenta que la oferta pública del doce

y que también tuvimos que trabajarla por lo tanto no es que llevemos trece y catorce sino que también

todo eso vale en la negociación incluso al señor oyarzábal seguro que le parecería bien por tanto señorías buen talante

optimismo para la negociación y sobre todo presentación de nuestras características de nuestras peculiaridades porque seguro que en ese caso tenemos
el éxito al alcance de la mano nada más y muchas gracias eskerrik asko

sí gracias buenas tardes gracias presidenta nosotros estábamos de acuerdo y de hecho seguimos estando de acuerdo porque esto no ha cambiado

por el grupo socialista nos parece perfectamente razonable todo lo que se plantea ahí el grupo socialista proponía que este parlamento instara

una amplia oferta pública de empleo para el profesorado de la enseñanza pública a fin de que se puedan corregir los crecientes índices de interinidad actualmente existentes

nos parecía razonable pero nosotros con nuestra enmienda hemos querido ser más concisos y apuntar algo que pensamos que este gobierno vasco debe hacer que es

intentar negociar con el gobierno de españa y era lo que hemos propuesto con nuestra enmienda

que rebaje de forma sustancial la tasa de interinidad actualmente existente es decir que negocie con el gobierno de españa las tasas de reposición para incrementarlas este era nuestro planteamiento y de hecho pensábamos que

llegar a algún tipo de acuerdo transaccional con el grupo socialista finalmente no ha sido así porque el grupo socialista ha decidido firmar una transaccional

a la necesidad de negociar con el gobierno de españa algo que nosotros consideramos algo absolutamente fundamental evidentemente eh bildu no se lo ha permitido

no ha querido pero es lo que nosotros pensamos que debe no solamente

que ha preferido firmar con el grupo eh bildu esa transaccional donde en ningún momento se plantea instar al gobierno vasco a negociar con el gobierno de españa que era lo que nosotros

nos proponía llegar a algún tipo de acuerdo tanto con ellos

popular en la que se propusiera instar al departamento de educación del gobierno a negociar de forma urgente con el gobierno de españa la posibilidad de incrementar la tasa de reposición al objeto de aprobar una ope para el sistema educativo que rebajara de forma sustancial la tasa de interinidad actualmente existente esto para nosotros nos parecía correcto y estamos dispuestos a incluso firmar siempre y cuando la última frase que también nos proponía no se incorporase se proponía añadir lo siguiente todo ello sin perjuicio de que se aprueben y convoquen las ofertas ya anunciadas por el departamento nosotros no hemos aceptado porque

y porque venía a posponer para más adelante las posibles negociaciones con el gobierno de españa de hecho esto que se nos ha ofrecido a nosotros lo que finalmente han firmado ambos grupos el grupo nacionalistas vascos y el grupo popular han firmado una transaccional en la que no se propone instar a este gobierno a negociar con el gobierno de españa sino que lo que finalmente se propone es que este parlamento dé

el compromiso anunciado por la consejera de educación por lo tanto no vamos a apoyar ni una transaccional ni la otra y vamos a defender y votar nuestra enmienda de totalidad lo cierto es que el departamento ha anunciado dos opes que se aprobarían a finales de año y que se celebrarían en el verano

central de cubrir las tasas de reposición del diez por ciento en dos mil catorce y cincuenta por ciento

nos parecen unos criterios claramente insuficientes

pero sí que se negocie por lo tanto ya digo que por esto no vamos a

según los propios datos del departamento en dos mil doce se jubilaron por distintas causas cuatrocientos sesenta y cuatro docentes en dos mil trece otros cuatrocientos setenta y uno

en dos mil quince cerca de seiscientos y aún más en los próximos años esto significa que desde dos mil doce hasta dos mil quince solo teniendo en cuenta las jubilaciones se perderían

y teniendo en cuenta lo dicho por la consejera se sacarían a ope cerca de trescientos cincuenta plazas a este dato se suman las tres mil cuarenta y cuatro plazas pendientes en base al acuerdo de mesa general de dos mil nueve es decir el gobierno vasco

mediante la convocatoria de trescientos cincuenta algo que nosotros consideramos absolutamente insuficiente tal como aquí se ha dicho y es algo que creo que hay que tener en cuenta euskadi cumple los objetivos de déficit y puede perfectamente o debería

esas cifras y convocar más plazas eso sí siempre que lo negocie con el gobierno de españa y haya un acuerdo para ello y es lo que nosotros proponíamos

de la interinidad que va a seguir aumentando cada año y más en estos años con un número de jubilaciones muy alto ya que la edad media de los profesores y maestros es

es aumentar la precariedad en el empleo que es una forma de recortar derechos en fin por todos estos argumentos nosotros lo que vamos a hacer es nuestra enmienda de totalidad y rechazar las enmiendas transaccionales que se han firmado nuestra enmienda de totalidad al igual que la enmienda de transacción firmada y promovida por la señora celaá también tiene vocación de alcanzar la mayoría de los votos y que pueda salir adelante en todo caso eso ya es cosa de ustedes

de manera breve para explicar

a respaldar una enmienda de transacción firmada con el grupo nacionalista porque efectivamente coincidimos con el grupo proponente con el grupo socialista

la señora celaá explica en su propia iniciativa y la mejor manera de mejorar las condiciones de trabajo por supuesto la mejor manera

efectivamente la de tratar de dar estabilidad mejorar las condiciones de trabajo pasan por dar estabilidad a las plantillas

estabilidad en el puesto de trabajo que nosotros desde luego defendemos que estamos exactamente igual de preocupados que ustedes en

la tasa tan enorme de interinidad de la educación vasca pero efectivamente siendo

necesitamos fijar las plantillas que necesitamos además que los profesores

tengan esa estabilidad en el puesto de trabajo para compartir para

para generar equipos también de trabajo en los propios centros

que son vitales para llevar a buen puerto los proyectos educativos necesariamente tenemos que hacerlo de acuerdo a las leyes de acuerdo a la normativa vigente y por eso nosotros queremos respaldar las opes planteadas por el departamento dentro

del marco normativo vigente y efectivamente creemos en unas abiertas creemos en la necesidad de ofertas públicas de empleo abiertas que aporten garantías y seguridad a todas aquellas personas que decidan realizar un esfuerzo preparar oposiciones prepararlas y presentarse a unas oposiciones que en nuestra opinión es fundamental que reúnan todas las garantías tenemos que ofrecerles todas las garantías y efectivamente también respetar las tasas

esperamos que en el dos mil dieciséis no haya limitación en las tasas de reposición es decir que estamos ante un horizonte que nos va a permitir yo creo que

abordar este proceso sin ningún tipo de limitaciones y desde luego que sí estoy de acuerdo y desde luego mi grupo ve razonable señora celaá que el gobierno vasco que el departamento de educación trate de llegar a un acuerdo negociar

explorar las posibilidades de aumentar esa oferta pública de empleo en todo caso no paralizar las que en este momento se están preparando busquemos

con esta propuesta del gobierno con las planteadas ya por el gobierno y veamos cuál es de verdad la oportunidad la posibilidad de negociar y buscar un acuerdo con el gobierno de españa no el enfrentamiento como buscan otros un acuerdo con el gobierno de españa que nos permita abordar una oferta pública de empleo en el marco de la ley reuniendo además efectivamente

creemos que es preciso buscar un acuerdo un acuerdo además el mayor consenso posible a la hora de abordar yo creo que un problema en el que todos

aportar reducir las tasas de interinidad es algo que nos compromete a todos pero efectivamente este gobierno lo tiene que hacer en el marco

eskaintza bat egin dizut zuk ez duzu onartu solamente le proponía que a lo que usted planteaba le añadiese dentro

del ordenamiento vigente exclusivamente usted no ha aceptado usted sabrá por qué

habla de convocar opes dentro del marco normativo vigente y este es un aspecto fundamental

para quien prepare esas pruebas deba de contar con todas las garantías de que el proceso sea válido

hoy no se ha podido poner bien hay una cosa que está clara que por parte del gobierno por parte del grupo nacionalista y por parte de otros grupos

para reducir la interinidad no sé si realmente todos podrían decir lo mismo escuchados algunos discursos o algún discurso a mí me genera muchas dudas

y otra a principios de dos mil quince y para terminar también en esta primera parte

creo que queda más que claro que es una oferta de empleo

dentro de los máximos que se puedan alcanzar y por supuesto dentro con la seguridad jurídica que se necesita

la normativa vigente no tiene recorrido no tiene ningún recorrido creo que no podemos o debiéramos de aceptar todos

señora celaá usted ha dicho que piden al gobierno que haga lo que pueden hacer que es lo que ustedes pudieron hacer en referencia a los mil quinientos once plazas del dos mil uno yo

no consigo entender muy bien entonces había una tasa de reposición una tasa de reposición puesta por el gobierno del partido socialista era del diez por ciento

dentro de la tasa de reposición no sé si es que estaban porque no había ninguna otra ope convocada etcétera aquí también se podría aumentar el número de plazas si se la quitamos por ejemplo a osakidetza cosa que creo que nadie pretende

creo yo entonces me tiene que explicar o si era ya la tasa de reposición por lo tanto ustedes lo que hicieron fue simplemente aplicar dentro de la tasa de reposición la ope lo que podían hacer

exactamente la misma que ahora diez por ciento puesta por ustedes o sino dice que negociaron pero negociar

es una prevaricación clara por lo tanto me gustaría que me explicase esa negociación si fue contra ley y entonces cómo se posible que el gobierno del estado no recurriese no era la circunstancia yo creo que no yo creo que contra ley no irían no prevaricaron supongo pero bueno me gustaría que me explicase

si una vez la tasa de reposición no tiene mucho sentido que a este gobierno usted le diga que haga lo que usted no pudo hacer es decir salirse de esa tasa y si lo que está diciendo es lo otro pues me imagino que tampoco le estará pidiendo

ni al gobierno del estado que se salte la ley ni que prevarique yo me gustaría que me aclarase esa cuestión

los términos hemos estado hablando yo creo que

y procurará seguir negociando ahora mañana y después

creo que a ningún gobierno le apetece estar pudiendo tener qué ofrecer no ofrecer porque sí

que mucho más contento estará por lo tanto en ese sentido tampoco creo que las dudas que a usted le suscitaba lo que nosotros planteábamos pues

en cualquier caso lo que sí nosotros décimos es que queremos que haya ope queremos que haya opes y queremos que haya opes con el máximo de plazas posible

la señora consejera y queremos que haya opes en el tiempo para que efectivamente

se vaya reponiendo pues todos los datos que ustedes han dado aquí

sí que hay que decir una cosa parece que oyendo algunas intervenciones dice es que con quinientos vamos a tener que hacer

una cosa es que sean ya plazas fijas y otra cosa es que haya interinidad

en cualquier caso que lo que queremos es que no haya esa interinidad esa eventualidad

por lo tanto precisamente en esa línea es en la que el gobierno planteó sus propuestas

yo ya les he dado bastantes datos resuelvan ustedes la incógnita lo que sí le puedo decir es que nosotros jamás hemos actuado contra legem nunca no hemos prevaricado

resuelvan ustedes la incógnita porque claro si yo le tengo que dar absolutamente toda la receta de cómo gobernar pues oiga entonces tenemos que cambiar las posiciones

que negocie con el gobierno de españa pero señor maneiro pero si eso es procedimental eso es una cuestión procedimental

porque mala posición negociadora tiene aquel que no es capaz de suscitar en el interlocutor

de que el interlocutor puede perder en la negociación mala posición negociadora y si naturalmente lo que nos dedicamos a hacer es decir

la posición de saque que tiene este gobierno que no es otra sino afirmar el diez por ciento para todo lo que ha dicho montoro y el cincuenta por ciento para lo que sigue diciendo malísima posición por lo tanto saquen ustedes la incógnita

pero es que los datos ya los hemos venido aportando bueno lo primero que le falta a este gobierno naturalmente es un acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los docentes

nos ha dicho que tenía un acuerdo desde luego con los grupos parlamentarios no lo tiene acuerdo político no está de momento pero a lo mejor lo tiene

esto le falta y los agentes sociales los representantes de los trabajadores han de tener y esto sí que es

esto sí que es legem realmente tienen que tener voz

por lo tanto señorías esto es posible la negociación tiene que estar abierta y además

o es que nos vamos aquí precisamente a poner fácil vamos a poner aquí desde aquí fácil la negociación para que los demás se sientan cómodamente sentados y digan sí sí el diez el diez es que nosotros tenemos alguna voluntad de que sea el diez

exactamente eso o tenemos la voluntad contraria y si tenemos la voluntad contraria por qué no pelearla

dónde está porque fundamentos para pelearla fundamentos para la negociación tenemos más que de sobra porque los índices de interinidad que tiene el sistema educativo vasco que le impiden mejorar su calidad son incomparables a cualquier otra comunidad y la razón

pero bueno pueden probablemente ustedes también las pueden hallar porque tienen

el gobierno tiene absolutamente todos los datos por tanto esta es una cuestión

eh bildu con quien yo he transado diga no se puede a mí no me ha dicho nada yo lo pasé como bien sabe el señor maneiro lo pasé así pero por qué cuando uno quiere llegar a una posición de consenso ha de poner trabas para hacerlo

no dice y con cuales quiera otras instancias que estén implicadas en el procedimiento por qué no cuáles son esas otras instancias el gobierno de españa

y a lo mejor otras también pero lo que les quiero decir señorías es que uno no puede partir de la base de que como ya se ha dicho no oiga las posiciones hay que debatirlas y hay que trabajarlas y hay que contrastarlas y razones

y probablemente con tenacidad y con razonamiento se pueden conseguir muchos mejores resultados nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea

señora celaá la que ha dado el dato de lo que hizo usted ha sido usted yo no le he sacado el dato sino que ha sido usted

como único argumento para justificar la propuesta que hace hoy por lo tanto si ese es el único argumento para decirle al gobierno que haga algo diferente a lo que ha dicho que va a hacer pues como mínimo tendría que haberlo aclarado

no hay más de las dos opciones que había me dice usted que elija

si elijo la primera es que era la tasa de reposición por lo tanto si usted aplica la tasa de reposición por qué dice al gobierno

primera cuestión segunda cuestión si lo que hizo fue negociar fuera de la tasa de reposición es negociar contra ley porque no era modificar

fue a pico una cantidad diferente por lo tanto si lo que me está diciendo es que haga eso creo que no

que no se puede hacer y automáticamente por eso se ha negado a firmar la propuesta que yo le hacía de dentro del ordenamiento vigente pero es que además sabe que el recorrido que tenía sería cero

como ve elijo pero de lo que usted dice ninguna de las dos elecciones me sirve absolutamente para poder justificar ningún tipo de negociación ni para poder hacer ningún tipo de fuerza negociadora en otro ámbito

dicho esto ha dicho otra cosa mire esta ya me

y ha dicho que no pongamos fácil la negociación oiga señora celaá la única forma de que no nos pase estas cosas sabe cuál es que no lo puedan hacer en madrid

ni legislación orgánica ni legislación básica la única porque la tasa de reposición la pusieron ustedes la pusieron ustedes el cien por ciento luego el treinta por ciento luego el quince por ciento y luego el diez por ciento y el partido popular continuó con la tasa del diez

lo que no nos puede decir ahora es sean ustedes muy valientes de hacer no mire usted cuando ustedes dicen

de esto que no podemos hacer lo que tenemos que hacer en este país e incluso ustedes mismos reconocen los grandes problemas

se plantean en la sanidad etcétera e incluso

dijo que estaba dispuesta a hablar para modificar el tema de la legislación básica bueno pues ya veremos ahí está la ponencia de autogobierno por lo tanto esto de negocio a ver según quién esté es mejor o peor que no

va a seguir así mientras no cambie esta cuestión eta hau esanda

buenas tardes presidenta señorías señora consejera presento en nombre del grupo popular esta moción consecuencia de la interpelación que el pasado viernes día diecisiete presentábamos a la señora consejera isiltasuna mesedez referente a un antiguo

más del gobierno el abastecimiento de zuia urkabustaiz también llamado abastecimiento del alto baias estos municipios sufren un déficit sistemático en época de estiaje con el regular a veces nulo en algunos de sus núcleos obligando al suministro con camiones cisterna que hace peligrar seriamente su desarrollo socioeconómico esto lo decía un portavoz del grupo nacionalistas vascos en el año dos mil uno en el congreso de los diputados en el dos mil uno la necesidad

antigua no porque lo diga el grupo popular sino porque es un sentir

los sufren y de todos aquellos que conocemos este problema

de álava como el gobierno vasco y también se llevó al congreso de los diputados cuando se debatía el plan hidrológico nacional que luego fue derogado

que plantea una posible solución para su abastecimiento

ratifica por unanimidad dicho anteproyecto y además solicita a la dirección de aguas de aquel momento la máxima

además se edita un boletín municipal donde se anuncia que el gobierno vasco proyecta una infraestructura que garantiza el abastecimiento de zuia y urkabustaiz y especifica su localización su capacidad los litros por segundo que corresponden a cada municipio como ven año dos mil seis año previo a las elecciones municipales y se dedican a lanzar mensajes que por fin el gobierno vasco venía a solucionar un antiguo problema en enero

publica la convocatoria y las bases del concurso para la redacción del proyecto

se adjudica la redacción del proyecto a la empresa

con un plazo de ejecución de nueve meses la señora viceconsejera responsable de medio ambiente y ordenación del territorio en aquel momento

hoy consejera informaba por escrito que estarían en condiciones de licitar las obras en febrero de dos mil ocho para la cual ya habían realizado las reservas presupuestarias oportunas señorías como les decía en la interpelación estamos en octubre dos mil catorce

está sin ejecutar en la interpelación preguntábamos a la señora consejera cuáles habían sido los motivos por los que no se había ejecutado

porque su compromiso parecía bastante firme pero

la señora consejera apelando a mi profunda ignorancia me decía usted señora lópez de ocariz

fue declarada de interés general en diciembre de dos mil cinco y que por tanto corresponde al gobierno central la ejecución de esta obra pero es que no lo sabe señora ocariz me repetía pues no no lo sabía porque efectivamente consultado el ministerio esta obra nunca fue declarada de interés general nunca

nunca fue declarada de interés general sí que en aquellos presupuestos se metió el grupo nacionalistas vascos metió una enmienda en los presupuestos

pero nunca nadie se interesó después por esta enmienda nunca se interesó nadie por esta obra pero es que usted señora consejera lleva dos años casi en el gobierno

por lo tanto nuevamente una vez más nos encontramos con que la señora consejera

pues responde con evasivas con algunas cosas que no se ajustan a la realidad y quiero ser

con una muy deficiente red de abastecimiento y que quien señora arregi en dos mil siete se comprometía a ejecutar este proyecto

redacción hoy echa balones fuera técnica en la que se ha especializado esta consejera y que

por eso desde el grupo popular hemos presentado esta moción instamos al gobierno vasco primero a que licite con carácter de urgencia las obras del proyecto

y en segundo lugar décimos que los presupuestos de dos mil quince

presupuestaria necesaria para la ejecución del proyecto constructivo de este abastecimiento

por el grupo nacionalistas vascos una enmienda que diluye la responsabilidad y el compromiso adquirido por la señora consejera en el dos mil siete y entonces hace un tótum revolútum del gobierno central a diputación los ayuntamientos

que no señorías que ya tenemos un compromiso del gobierno vasco del dos mil siete un compromiso

y que no hay vuelta atrás que esto es un compromiso del gobierno y si este gobierno quiere

presentamos esta moción y esperemos que los grupos de la cámara la apoyen nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

es que es si hoy vemos este asunto en el parlamento es porque se están perdiendo las buenas costumbres

intervenga un representante de la comarca exponga un problema que afecte a los vecinos y solicite la intervención de la diputación en la resolución del mismo y esa solicitud suele aceptarse a veces no de buen grado pero suele aceptarse señora lopez de ocariz

que se debatiera en el pleno de tierras esparsas celebrado en zuia

junio por tanto si se hubiese actuado como es costumbre esta obra debería realizarse por la diputación pero bueno situemos el asunto en su contexto

el mantenimiento de la red y alcantarillado el tratamiento y depuración de aguas residuales son competencias legales plenamente atribuidas

debe ser asumidas por estas de forma particular o asociada

y cuando después de veinticinco años no se ha resuelto el problema es que el asunto no es nada fácil partimos de la no disponibilidad

de la población durante los trescientos sesenta y cinco días del año de una población

entre los dos municipios y repartidos en más de veinte núcleos y concejos

casos es también un reflejo de uno de los problemas que históricamente conlleva el agua en araba

la dispersión de competencias entre distintas administraciones que provoca una descoordinación de actuaciones en araba tienen competencia en la materia los concejos

y como parece evidente es necesario coordinar todas las funciones que conlleva el ciclo integral del agua por eso hemos presentado una enmienda en la que proponemos

celebren los oportunos acuerdos para la financiación construcción y mantenimiento de las infraestructuras capaces de resolver este problema

institucionalización de un ente en el que participen todos para llevar a cabo la gestión

mientras eso no ocurra se deben instrumentalizar acuerdos o convenios en tal sentido

todo ello sin menoscabo de las competencia locales pero teniendo en cuenta el factor supramunicipal

poseen hoy no hablamos de saneamiento pero también existen infraestructuras de esta clase en estos municipios en la comarca que deben ser gestionadas y la construcción de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento requieren un gran esfuerzo inversor

la asignación de amplios volúmenes de recursos financieros y tecnologías cada vez más complejas de gestionar ayer mismo lo pudimos comprobar en la vista que hicimos al consorcio de aguas de urdaibai en este caso se trata de una balsa y de una estación depuradora de agua potable otra

una gestión que no pueden abordar correctamente por sí solos los pequeños municipios como zuia y urkabustaiz se necesita una gestión asociada y esa tarea los municipios deben apoyarse en la diputación foral que es quien debe facilitar los medios técnicos y personales para ello en este sentido

o no hemos sabido dar una respuesta correcta a esta problemática no existe en álava un ente que aglutine a estos municipios que pueda recibir unas obras de esta naturaleza

y a nuestro juicio con carácter inaplazable y entendemos que la construcción de esta o aquella infraestructura sobre todo las relativas al saneamiento para el cumplimiento de la directiva marco

no seremos nosotros quienes nos opongamos a la construcción de esta infraestructura

para resolver este problema bien desde los gobiernos locales de ambos municipios

mediante la elaboración de numerosos estudios proyectos investigaciones hidrogeológicas etcétera etcétera o bien desde la oposición

que tuvo continuidad señora lópez de ocariz en los años dos mil siete dos mil ocho dos mil nueve dos mil diez y dos mil once consta en el boletín oficial del estado por importe uno coma cinco euros para la construcción del embalse

actuaciones ambas que fueron torpedeadas desde distintas instituciones alavesas

pero señorías la inclusión de esta obra en los presupuestos de la comunidad autónoma

que no se arruine que se trata de evitar el despilfarro de recursos públicos que no se eche por la borda la ingente cantidad de recursos públicos que se destinan a este tipo de actuaciones por eso proponemos que antes de licitar las obras se resuelvan entre las diversas administraciones afectadas las siguientes cuestiones quién va a ser el titular de la concesión del aprovechamiento que todavía no está otorgada

que se decida quién va a expropiar los terrenos necesarios para ejecutar las obras y quién va a indemnizar a los afectados

o quién se va a encargar del mantenimiento y explotación de las instalaciones una vez terminadas

es cuando a nuestro juicio se puede hablar de incluir las previsiones presupuestarias para la construcción de las obras no tiene ningún sentido presupuestar la ejecución de unas obras

ni de los proyectos constructivos ni de los terrenos necesarios para su construcción y como esas cuestiones están en el aire sin concretar por eso no vamos a apoyar la iniciativa presentada por el grupo popular

pero preferimos quedarnos solos a suscribir acuerdos que no pueden ser cumplidos

muchas gracias señora presidenta con su permiso desde el escaño simplemente para decir que el partido socialista votará a favor

esta vez cumpla como consejera lo que no cumplió en su momento como viceconsejera muchísimas gracias eskerrik asko zaballos jauna

gracias señora presidenta en primer lugar quiero agradecer al grupo socialista y al grupo eh bildu el apoyo a la iniciativa y quiero aclarar algunos aspectos que ha dicho el señor aldaiturriaga hace bien señor

por lo menos en álava llevarlos a los plenos de tierras esparsas máxime cuando ese pleno

tengo que decir que nuestro grupo que comparte plenamente esa idea

a la junta de portavoces la presentó y fue a la junta de portavoces donde se decidió qué puntos iban a plenos de esparsas la junta de portavoces y entre ellos

nacionalistas vascos votaron en contra porque entonces su grupo en juntas estaba

y entonces desecharon llevar esta moción por lo tanta nosotros que seguimos manteniendo el interés de que el pleno de tierras esparsas se lleven asuntos

está en esa idea hablaba de la enmienda efectivamente ustedes presentaban una enmienda sistemática un corta y pega pero el interés

fue cero durante todo ese periodo nunca se preguntó qué hace qué va a ejecutar cuándo va a ejecutar ha hecho algo el gobierno nunca por lo tanto una enmienda sistemática de corta y pega pero el interés cero

en el dos mil siete tenía reservada la cantidad presupuestaria pues la señora oregi será quien tiene que pagar la obra

por lo tanto señor aldaiturriaga no demos vuelta a la tortilla y empecemos a ver quién paga porque claro usted dice que también nos lo decían hace unos días

hay disponibilidad económica el esfuerzo inversor es muy importante y no hay cantidad para poder soportar esas

pero es que yo tengo otra duda cómo desde este departamento sistemáticamente se dice que no hay

las obras que están pendientes de muchísimos años y este departamento a la vez está presentando macroproyectos

con inversión nueva y compromisos nuevos por ejemplo el servicio de saneamiento integral de la llanada con una inversión importantísima que también es otro puff para

yo no sé probablemente señora aldaiturriaga el departamento no le cuente todas las cosas pero en eso está la señora consejera

y quién los va a pagar oiga pues primero antes de lanzar el macroproyecto que fije y diga quién lo va a pagar y luego ya

anunciar aquí a bombo y platillo proyectos que luego los va a pagar no sabemos quién pues francamente es una manera de actuar sorprendente

este departamento se está caracterizando en estos dos años por hablar mucho y hacer nada y lo que nosotros intentamos es que por lo menos

por esta área también tenga algún resultado bueno y positivo para los ciudadanos y que se les resuelva los problemas de una vez problema como es el abastecimiento

estamos en el año dos mil catorce por lo tanto creo que es hora de que afrontemos las necesidades y las prioridades porque luego también el gobierno a mitad

de repente unos millónes para no sabemos qué cosas cuando hay necesidades básicas que llevan muchísimo retraso y están sin ejecutar nada más muchas gracias

de este problema la inclusión

estaba vinculado a la ejecución de unas obras que lamentablemente no fueron ejecutadas pese al compromiso político

por esa razón hemos incluido se trataba de una infraestructura hidráulica prevista en ese año que no ha sido ejecutada pese al tiempo transcurrido

que a día de hoy no existe en sentido jurídico estricto una obligación exigible a la administración general del estado más allá del contenido de la naturaleza política

lo que hoy traemos aquí pedimos el cumplimiento de esos acuerdos

y desgraciadamente se pone de manifiesto una vez más el incumplimiento de los compromisos adquiridos parece ser que la única manera de hacer esta obra va a ser construir esta obra con los recursos propios de los ciudadanos vascos y en este sentido

a esta iniciativa eximiendo a la administración general del estado de este compromiso es un mal negocio para este país

al incumplimiento de los compromisos adquiridos por la misma

el partido nacionalista vasco se ha ocupado muchos años y si no ha resuelto como digo es que el problema no tiene fácil solución y la implicación desde luego de todos los alcaldes del partido nacionalista vasco en esta resolución ha sido

estaríamos drenando recursos que bien pueden ser utilizados para satisfacer otras necesidades colectivas no estaríamos realizando una gestión eficiente en consecuencia estaríamos gestionando mal los recursos que ponen en nuestras manos los ciudadanos porque la secuencia de una correcta actuación administrativa

después se efectúa la elaboración de impacto ambiental cuando proceda como es este el caso

solamente la obtención de terrenos por expropiación no se puede realizar en menos de seis meses y la licitación

incluir esta partida en los presupuestos de dos mil quince salvo como digo para ponernos a la misma altura que otros

de compromisos suscritos señora lópez de ocariz no cuenta lo acontecido en estos últimos años hace un relato hasta dos mil ocho se ha parado ahí se olvida de que en ese relato en los presupuestos generales del estado estaban incluidos estos compromisos para la construcción de las infraestructuras

ustedes apoyaron un gobierno que desprogramó esta obra introdujeron los presupuestos dos mil diez

subvenciones nominativas millónarias para obras de infraestructuras hidráulicas en otros municipios de álava y están publicadas

a las cuales me remito si ustedes tanto el grupo popular como el grupo socialista hubieran estado realmente preocupados por resolver el problema de zuia hubieran actuado de modo diferente debieran de haber incluido las oportunas

en esos años dos mil diez dos mil once y dos mil doce como digo o bien haber

su ejecución en el seno de los acuerdos entre la diputación foral de álava y el gobierno a través de ura

han sabido o querido materializar y

señoras del grupo socialista y del grupo popular no tienen credibilidad en esta materia

que efectivamente nos exijan el cumplimiento de algunos compromisos

o unos partidos que llevan treinta y cinco años incumpliendo una ley orgánica como es el estatuto de autonomía besterik ez eskerrik asko